gracias señora presidenta efectivamente nos encontramos ante el trámite del decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley de conservación de la naturaleza del país vasco es decir estamos en este caso ante un supuesto de normación o legislación delegada cuyos límites son conocidos definidos y determinados tanto doctrinado como positivamente entre otras disposiciones en la ley de

estos límites en síntesis son respetar el límite temporal por el dictado del texto refundido ceñirse al ámbito o perímetro al que se refiere el contenido de la delegación

único sin incurrir en exceso en el ejercicio de la legislación de la delegación legislativa así la norma delegante se encuentra recogida en la disposición final primera de la ley

de la naturaleza del país vasco que literalmente dice lo siguiente se autoriza al gobierno para que en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor de esta ley refunda

la ley uno barra dos mil diez de once de marzo de modificación de la anterior

de la naturaleza del país vasco el texto refundido se limitará a integrar las citadas leyes en un único texto y

así como adecuar las remisiones internas de las leyes objeto de la refundición a la nueva numeración en cuanto al primero de los límites decir que efectivamente se han cumplido se han cumplido por los pelos dos días quedaban para finalizar el plazo por otro lado la ley habilitante establece unos límites muy estrictos entre los que se deberá mover el gobierno que deberá circunscribirse a integrar

así como adecuar las remisiones internas de las leyes objeto de refundición y corregir en su caso

estos límites de la delegación han sido a nuestro entender y asumiendo el criterio de la cojua en este asunto desbordados por la eliminación de la disposición

por lo tanto entendemos que esto coincidimos con el criterio de la cojua y no coincidimos con el criterio del gobierno

esta disposición establece también un régimen específico para quienes poseían una licencia de caza entre los años ochenta y seis noventa de tal forma que a estas personas se les permitió obtener la licencia de caza en el país vasco sin necesidad de realizar una prueba de actitud

la ley dos barra dos mil once de diecisiete de marzo de caza que explicita los artículos que resultan afectados por la derogación

que al establecer un régimen específico debía de ser específicamente derogada solamente en el caso de que el supuesto previsto en esta disposición adicional

por su inutilidad podría en su caso haber sido suprimida en la labor refundidora pero no consta en el expediente motivación específica que justifique la supresión en cuanto a la corrección de errores como ha dicho la señora consejera en el texto refundido

de mera técnica legislativa pero entendemos por ejemplo que en el artículo treinta y nueve se mantiene la locución etcétera una locución impropia de un texto legal y que obviamente carece de ningún mensaje

por otro lado en el artículo cuarenta se mantienen las siglas

de la más elemental técnica legislativa debería haberse sustituido por la denominación comunidad autónoma del país vasco señorías

desde el grupo socialista muy brevemente porque entendemos que este es un trámite legal que debe cumplir el gobierno una vez aprobada la modificación de ley de conservación de la naturaleza

esta modificación de ley viene de manos de las juntas generales de álava con una intención concreta que finalmente no se vio reflejada en dicha modificación por parte de quienes la promovieron desde el grupo socialista entendemos que se cierran puertas a actividades económicas que dañaban zonas protegidas se pone límites a quienes buscaban en las leyes y buscan en las mismas no respetar el medio ambiente

medioambiental que se han incluido en la ley entendemos que el gobierno cumple el mandato que le corresponde que es traer a la cámara vasca este trámite

es velar políticamente por que la ley se cumpla en la fusión de todas las leyes que se ha hecho
según ha dicho la señora consejera nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea maeztu jauna

más desde aquí no hemos venido aquí otra vez a debatir sobre la ley de conservación de la naturaleza que ya la debatimos estamos aquí para ver si la

las diferentes modificaciones de la ley lo habían hecho bien o no y estamos de acuerdo

lo han hecho bien como así los informes jurídicos lo dicen y además en cualquier caso lo que se ha hecho es una ley que como ha dicho mi antecesora en el uso de la palabra la señora rojo

muchas actividades económicas de una manera seguramente jurídicamente mucho más

y segura que como lo han hecho otras comunidades autónomas que como estamos viendo prohibiciones taxativas están siendo recurridas y ganadas en el tribunal constitucional en cualquier caso

nuestra satisfacción porque se ha hecho una fusión de una ley

para facilitar la unicomprensión del texto legislativo y no andar

y debatiéndolos y por otro lado creemos que ha sido muy oportuno y provoca nuestra satisfacción el hecho

que con un diccionario muy completo que seguramente va a permitir

sobre el tema y ha sido una modernización del texto que creo que con el tiempo alguien lo valorará como enormemente positivo muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

muchas gracias señora presidenta seré

todos los grupos parece que van a tomar en consideración la propuesta que nosotros hemos planteado y visto también

le parece bien dicha propuesta pero me van a permitir que

para modificar la ley de gobierno y entendemos que es una buena medida para mejorar el sistema democrático y de control que tenemos esta cámara no hemos planteado la ley de transparencia que afectaría a muchas más cuestiones pero sí entendemos que el que esta cámara que los grupos de esta cámara cuenten con los documentos

mejora sustancialmente la labor de impulso y de control del propio parlamento vasco entre otras cosas porque como hemos visto en el punto anterior

hay documentos hay anteproyectos del gobierno que van a la comisión jurídica asesora que emite un informe y luego el gobierno toma en consideración o no parte de esos argumentos de la comisión jurídica asesora pero que luego esta cámara sin embargo

no les da a conocer ese documento de la comisión jurídica asesora sobre qué

por el propio gobierno vasco por lo tanto nos parece que es un tema importante que no es un tema baladí que evidentemente facilita la labor

a la contestación del gobierno tenemos que decirle al gobierno que evidentemente ha dicho que no se opone pero que nos dice que en fin como que la propuesta esta queda un poco obsoleta porque existe ya la ley de transparencia en la administración central y es cierto que existe y es cierto que contempla muchas medidas

que los ciudadanos puedan tener de los fondos públicos pero no es menos cierto

no obliga a adaptarse a las comunidades autónomas hasta dentro de dos años es decir podríamos estar esperando en este parlamento por ejemplo en este caso concreto

a que esta cámara que prácticamente es acabada la legislatura a que esta cámara pudiera conocer o tener acceso a la información que estamos solicitando

con esta frase agradecer a todos los grupos la toma en consideración de esta proposición de ley y evidentemente como todas es mejorable

del grupo que apoya al gobierno entiende que todavía se puede mejorar mucho más con muchas más medidas

no duden que contarán con nuestro apoyo favorable muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna upyd taldearen ordezkaria den maneiro jauna zurea da hitza

propone el grupo popular y por eso votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley tal como se dice la modificación que se propone resulta necesaria a la hora de mejorar la labor de impulso y control al gobierno desde los grupos parlamentarios y a partir de ahí

de un par de artículos de la ley de gobierno compartimos lo que se propone nos parece

popular porque no parece lógico que los anteproyectos se remitan a diversos organismos y agentes implicados en el tema y no se remitan a los grupos parlamentarios el gobierno podría quizás decir que los anteproyectos son todavía

sujetos a modificaciones y es cierto pero lo cierto también es que dan una idea de por dónde va a ir el proyecto definitivo porque se supone que el gobierno tiene una idea clara del corpus del proyecto y las modificaciones que se vayan a introducir sobre ese periodo de consultas tampoco van a alterar ese núcleo

esa información por lo tanto puede ser interesante para los grupos parlamentarios que pueden empezar a trabajar sobre el anteproyecto incluso encargar a especialistas externos informes o aportaciones al mismo y de ese modo además podríamos tener una información más completa y podríamos

a realizar y también por razones de transparencia como señala el grupo popular cuando dice que por transparencia estaría bien tener acceso a los anteproyectos a la vez que se ponen en circulación en otros ámbitos ya digo que parece perfectamente razonable no parece

y definitiva palabra sobre la aprobación de la ley el parlamento pues sea el último en conocer cómo se ha ido trabajando en él qué modificaciones ha sufrido desde que se celebra el primer anteproyecto o que no tenga acceso o toda la información disponible efectivamente el gobierno ha dado el

proposición de ley del grupo parlamentario popular y lo cierto es que en este criterio del gobierno señalar básicamente dos cosas que el gobierno está firmemente comprometido con el principio de transparencia

que realmente puedan ser útiles para avanzar en este objetivo y por otro lado hace referencia a la ley nacional de transparencia y hace también referencia

empezar a debatirla evidentemente no vamos a comparar esta limitada proposición de ley que nos plantea el grupo popular con la ley de transparencia nacional

y que no se incorporaron o con las medidas de transparencia que debería recoger la futura ley de administración pública vasca pendiente de aprobarse pero

las cita sí que debemos señalar alguna cosa sobre estas cuestiones

queremos decir que esta ley se quedó muy corta lejos de los parámetros europeos y menos de lo que merecen en nuestra opinión los ciudadanos ni considera

como un derecho fundamental de los ciudadanos ni acepta a la totalidad de las empresas que reciben dinero público independientemente

y en relación a la ley de administración pública vasca que debería remitirse a este parlamento y que está incluido en el calendario legislativo y que el gobierno cita en su criterio favorable hay que decir que no ha llegado que no hemos podido debatirla

absolutamente indispensables podemos recordar también que fuimos nosotros fue upyd

una ley de transparencia como tal y que la trajera a este parlamento antes de seis meses donde pretendíamos incorporar una serie de principios y medidas fundamentales que esta ley recoger siendo la propuesta finalmente rechazada y aprobándose una transaccional de mínimos en su lugar y desde luego también podemos decir que siguen pendientes

en multitud de campos sin ir más lejos en este mismo parlamento también pero también en lo que se refiere

a otras instituciones y en lo que se refiere a las empresas públicas o participadas por las diferentes instituciones faltan medidas de transparencia que habría que adoptar

en este mismo pleno en un punto posterior debatiremos digamos que prácticamente en la práctica sobre la cuestión debatiremos sobre la empresa ibarzaharra y la transparencia en las empresas públicas veremos si el grupo que sustenta al gobierno pues tal como se dice en este criterio favorable está firmemente comprometido con el principio de transparencia con su voto si finalmente también vota a favor de nuestra proposición no de ley que es una proposición no de ley que tiene como objetivo ganar también en transparencia

al debate de hoy ya digo que nos parece perfectamente razonable nos parece un paso

en la buena dirección y por eso nuestro voto favorable gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den mendia andreak dauka hitza

egun on guztioi mila esker mahai buru andrea en esta proposición de ley del grupo popular también el grupo socialista votará

de similares características o por lo menos con un objetivo similar se presentó

es una iniciativa que compartimos puede facilitar el trabajo de los parlamentarios y contribuir además a una cosa que a mí me parece muy interesante y es a agilizar los trabajos en esta cámara

un anteproyecto de ley podemos tener más tiempo para ir elaborando las posibles enmiendas ir estudiándolo ir consultándolo lo que no queda claro en la iniciativa presentada es el momento procedimental en el cual solicita esta cámara con esta modificación de ley

porque ustedes hablan de que se remita el expediente completo que entra en la comisión jurídica asesora con todos los informes memorias etcétera cosa que compartimos los socialistas pero si nos llega en ese momento procedimental como máximo tendremos dos meses

prácticamente definitivo con pocos cambios sin embargo en la iniciativa presentada en el congreso de los diputados el momento procedimental era diferente era anterior

pero es cuando se eleva el anteproyecto al consejo de ministros para que este sea aprobado traducido al gobierno vasco sería el consejero o consejera da una orden de inicio se elabora un borrador sobre el esquema

de impulso político del consejero y se hace un borrador que se aprueba ese borrador aprobado que tiene ya carácter de anteproyecto es el que es remitido en la fase de información pública a todos los agentes concernidos con ese anteproyecto de ley

en qué momento procedimental deseamos pedir al gobierno

en ese momento en el que son informados y consultados los órganos el

diputaciones eudel todos aquellos que puedan tener un interés

o deseamos que nos lo envíen al final cuando va a entrar en la cojua ese es un debate que es diferente y por lo tanto

esa es una cuestión a tener en cuenta porque aquí se habla de la modificación de la ley de gobierno sí pero no hay que olvidar que también existe una ley

al gobierno cómo se tienen que elaborar las normas de rango general es decir las leyes y los decretos por lo tanto yo creo que

se pueden hacer algunas aportaciones o por lo menos fruto del debate que surja

puede ser una de ellas desde luego del anteproyecto que hemos conocido de administración pública vasca que se ha colgado en irekia y que hemos tenido posibilidades de leer la transparencia que propone el ejecutivo actual en el aspecto de dar a conocer las normas que están haciendo

en el momento en el que se vayan a elevar al consejo de gobierno lo cual es igual a nada

y a nada en posibilidades de cambio por lo tanto yo creo que también ahí hay un amplio campo de mejora y por lo tanto es oportuna esta ley porque va a aportar

en un tiempo anterior el que podamos tener conocimiento de esas leyes para terminar porque tampoco

por todas las razones que hemos expuesto a la toma en consideración por la misma razón también que votamos en el congreso de los diputados a favor de la misma muchas gracias eskerrik asko mendia

como un ejercicio de honradez democrática lo decía mi compañera laura mintegi

es algo fundamental desde el punto de vista de la necesidad de hacer política de otra forma planteamos cambiar la cultura democrática y hacer política de otra forma

este punto de vista lo que ahí plantean ustedes es insuficiente a pesar de ello nunca nos negaremos a dar pasos en esa dirección lo que hoy se plantea

un pequeño paso muy pequeñito por lo cual votaremos a favor gu prest

hori da lehenengo premisa la información no es una materia pasiva la información es una materia dinámica y la información es creadora de opinión

babestu egiten ditu y como el movimiento se demuestra andando me van a permitir que comparta con todos ustedes diversos ejemplos que vienen a corroborar que los compromisos adoptados por el gobierno vasco en estos ámbitos se materializan

en la primera comparecencia ante este parlamento del consejero y portavoz

para mejorar la colaboración entre el gobierno y el parlamento y prometió hacer un seguimiento de las obligaciones impuestas al gobierno a través de las diferentes

que los grupos de la cámara a través de una proposición no de ley solicitamos al gobierno la elaboración de un informe relativo a la situación y al grado de cumplimiento

y de las resoluciones aprobadas por el parlamento pues bien

de estudiar dicho informe y en total saben ustedes que se analizaron quinientos veintitrés iniciativas con la presentación de este informe

que avanzan y profundizan en la transparencia y en la colaboración entre el gobierno y el parlamento como señalaba al inicio de mi intervención la segunda razón

es el compromiso y la apuesta decidida del gobierno con la transparencia son diversos los instrumentos o las iniciativas de las que podemos hablar

la mencionada ley de la administración pública vasca que saben ustedes que su anteproyecto incorpora obligaciones y derechos en materia de transparencia

desde el ámbito del derecho al acceso a la información pública también con el objetivo de hacer de la nuestra una administración más transparente y cercana a la ciudadanía el consejo de gobierno el pasado veintinueve de abril

las instrucciones sobre buenas prácticas en la contratación de servicios de tal manera que todos los contratos independientemente de su cuantía deberán inscribirse en el registro público de contratos y podrán ser consultados por la ciudadanía que esto es lo importante finalizo este breve repaso con la referencia a los trabajos emprendidos por el departamento de administración pública y justicia para elaborar y remitir al parlamento vasco un plan

de open data antes de que finalice el presente período de sesiones en coherencia con lo solicitado recientemente por este parlamento al gobierno ahora bien

queremos advertirles que la iniciativa que hoy debatimos corre el riesgo como se mencionaba anteriormente de quedarse obsoleta rápidamente y es más

vasca de la lectura del anteproyecto de dicha ley que por cierto como se ha mencionado está colgada en irekia constatamos de esa lectura que el contenido

que la ley de transparencia del estado evidentemente no fija derechos fundamentales los desarrolla los derechos fundamentales los fija la constitución las leyes los desarrollan y por lo tanto

a una ley digamos ordinaria el que no fija derechos fundamentales

digamos hacer la critica que quiera pero no es lo procedente al partido socialista

en la ponencia discutiremos si el trámite más adecuado para recibir esa información es antes de que el gobierno o a la vez el gobierno lo remite a la cojua

que cuando se remite a la cojua ya están todos los informes previos y preceptivos de todos los organismos sociales digamos entre comillas que tienen que dar la opinión y por lo tanto

que nosotros no vamos a hacer evidentemente de cuando sea el momento adecuado

el quid de la cuestión de esta ley y a bildu

discursos y hechos hay discursos y hechos hay palabrería y hechos todo lo que los demás hacen está muy mal pero ustedes

yo qué quiere que le diga mucha palabrería pero ley de transparencia la que aprobó el gobierno del partido popular esa ley que va a obligar a todas las administraciones públicas a cumplir esos objetivos quizás un plazo demasiado

a las comunidades autónomas y administraciones de dos años para adecuarse a esa ley

como los que se están aplicando en otras administraciones y al partido nacionalista vasco

proposición de ley porque algún día quizás entre aquí el proyecto de ley del gobierno pues cuando entre ese proyecto de ley quizás lo veamos o quizás no lo veamos de momento la que se está tramitando es esta

zure baimenarekin damborena jaunari erantzuteko mire usted señor damborenea

el señor maroto dijo que la transparencia está unida a la credibilidad lo dijo

creo que era el veintiuno de noviembre usted cree qué credibilidad nos puede merecer usted

nos dice a nosotros que no tenemos palabras sino hechos cuando ustedes

la misma formulación que plantea la proposición de ley le dicen que no y ustedes nos vienen aquí

desde luego la credibilidad de eh bildu es mucho mayor que la del partido popular besterik ez

mila esker presidente andrea egun on guztioi anunciarles que los dos grupos proponentes de las dos

acuerdo de enmienda transaccional que entiendo que les será pasada a sus señorías ahora mismo desde que

a la consejera de cultura hace no recuerdo exactamente las fechas ya con este parón

de las explicaciones aportadas por la propia consejera era necesario que este pleno se pronunciará también a través de una votación en relación a los acontecimientos que están sucediendo entorno al proyecto de la capitalidad donostia san sebastián dos mil dieciséis

que han sucedido algunas cosas significativas desde entonces es verdad que el propio lehendakari se ha reunido con el alcalde de san sebastián y ha hecho el propio lehendakari también después unas manifestaciones no solo de respaldo del proyecto

mostrando su preocupación con la situación y apostando por el impulso del propio proyecto algo que es razonable y que nosotros aplaudimos y respaldamos como actitud por parte del propio gobierno vasco a través del lehendakari

que los grupos municipales del ayuntamiento de san sebastián se han hecho

peyorativo se han hecho una foto juntos eso es lo que han hecho y han firmado también han acordado también una declaración institucional

voy a ser un poco crítico con la misma no crítico por el contenido sino crítico con el fondo que aunque parezca lo mismo

llegar al entendimiento en las cosas fáciles es

en la generalidad y las declaraciones institucionales en este caso la aprobada en el ayuntamiento de san sebastián suena bien pero hace falta también que se materialice en hechos y en cosas reales y la realidad es que este martes

y acordaban una declaración institucional ahí la foto los hechos es que por la tarde de ese mismo martes y el miércoles el alcalde de san sebastián que entre otras funciones es el presidente del patronato y entre otras funciones

el alcalde de san sebastián anunció unilateralmente el nombramiento de una persona que bien es cierto que con carácter temporal iba a asumir o

para asumir la dirección general del proyecto insisto con carácter unilateral es verdad que con el apoyo de un grupo del ayuntamiento de san sebastián

a alguno y les confieso que me queda a mí es que de esa buena voluntad expresada

de los grupos municipales para que a pesar de lo que estaba sucediendo hubiera voluntad y fueran capaces de llegar a un acuerdo a través de un texto

somos muy críticos por su gestión resulta que a las primeras de cambio es

en papel mojado por lo tanto el consenso es una mera retórica y la rectificación del camino llevado hasta ahora

de gestionar este proyecto que es el alcalde de la ciudad

es como les digo papel mojado la realidad es que a día de hoy no existe

un pliego no existen unos requisitos unas

para conseguir que esa temporalidad en la dirección general se convierta en una decisión

para que alguien asuma el liderazgo a través de la dirección general del proyecto

a día de hoy como no existe tampoco un nombramiento

para nombrar una dirección de comunicación que como todos entendemos es fundamental en un proyecto de estas características

para el nombramiento de una dirección de proyectos como ustedes saben todavía no tenemos

tenemos un mero borrador que ni tan siquiera llega a eso

todo sigue sonando a pesar de los sustos que hemos

todo sigue sonando a demasiado improvisado demasiado amateur por parte de quien tiene la responsabilidad primera y de gestionar este proyecto por eso es tan importante y por eso creemos que es muy oportuna esta moción cuando insta al gobierno vasco a que ejerza a que garantice

no existe en la gestión del proyecto en el liderazgo del proyecto a que el gobierno vasco

garantice vele porque quién vaya a ser

o la próxima director o directora general del proyecto responda a unos criterios de profesionalidad contrastada y responda a unos criterios de capacidad contrastada para impulsar un proyecto que está dicho de una manera suave estancado y eso es lo que se insta

las manifestaciones realizadas por el lehendakari por la consejera hoy puedan ser ratificadas también por este pleno y compartidas también a través de esta votación

que la consejera habida cuenta de la situación de excepcionalidad por la que estamos atravesando comparezca en pleno cada cierto tiempo para explicar perdón

para explicar el desarrollo de los trabajos del patronato de la fundación porque nos parece oportuno también que un proyecto de estas características

en todo caso que la consejera comparta en este parlamento cuál es el papel que está desarrollando el gobierno y cuál es la actitud que está manteniendo en el tercer punto de esta enmienda de transacción se pide también al resto de instituciones faltaría más que se impliquen para hacer posible que el proyecto salga adelante

y último y cuarto punto se literalmente este pleno respalda y se adhiera a la declaración institucional aprobada por el ayuntamiento de san sebastián el pasado veintinueve de abril por muy retórica que suene puede y merece ser avalado en este pleno en definitiva y termino ya señorías alguien

me decía hace poco alguien del ayuntamiento de san sebastián que

el alcalde había manifestado el alcalde de san sebastián había manifestado dicho esto literalmente

cuando accedió al gobierno de la ciudad cuando accedió a la alcaldía de san sebastián manifestó que

no creía en el proyecto de la capitalidad y que para convencer a la izquierda abertzale para arrastrar

tenía que entrar su gente a gestionar el proyecto de la capitalidad

quizás el origen de muchos de nuestros males está ahí es que esto no depende de

por eso señora consejera es tan importante su papel para que usted aporte esa profesionalidad que sabemos que tiene

que quienes gestionen quienes dirijan técnicamente este proyecto no respondan a ningún color no respondan a ninguna bandera en todo caso

de la ciudad de san sebastián o más concretamente al proyecto de capitalidad en eso confiamos señora consejera y por eso

gracias presidenta lehendakari consejeras consejeros señorías

en torno a la capitalidad europea donostia dos mil dieciséis en estas últimas cinco o seis semanas

el grupo socialista interpelaba al lehendakari sobre cuál era el propósito de su gobierno en relación con las acciones concretas a plantear para desarrollar dicho proyecto y realizábamos esa interpelación porque el corazón técnico de la capitalidad se había disuelto como un azucarillo en un vaso de agua entre dimisiones y ceses de un equipo

ha constituido una amenaza más identidad además al proyecto de capitalidad europea de la cultura en febrero de este mismo año dos meses antes de nuestra interpelación

que siguiendo las recomendaciones de la comisión de control y asesoramiento de las capitales europeas de la cultura se había instado a los cuatro niveles de gobierno

en la organización del excelente programa artístico que es lo que permitió ganar la candidatura

que se había trabajado duro para conformar un equipo técnico capaz de reconducir de manera satisfactoria la situación del proyecto

para desarrollar y gestionar mejor el proyecto hoy aquel equipo

y los socialistas que hasta en cuatro ocasiones en esta cámara en sesión plenaria hemos señalado cuáles eran las claves de la deriva que llevaba el proyecto y hemos realizado siempre una crítica constructiva porque hemos demostrado con hechos y seguimos mostrando además nuestro compromiso en este proyecto de cultura para la convivencia

hemos intentado aportar ideas y propuestas con el ánimo de sumar de ayudar y de hacer realidad el proyecto cultural europeo san sebastián dos mil dieciséis

pero en la política y en la responsabilidad institucional hay que hacer en muchas ocasiones de la necesidad virtud y por eso tras las respuestas de la consejera a nuestra interpelación y tras la declaración institucional aprobada por el ayuntamiento de donostia san sebastián el treinta de abril apoyando el proyecto los socialistas

no contravenía ningún acuerdo ni consenso conseguido más bien todo lo contrario nuestra iniciativa esta moción que presentábamos y la enmienda transaccional que también les hemos planteado a todos ustedes resulta hoy más necesaria que nunca con esta iniciativa lo que pretendemos por un lado es que el gobierno vasco garantice la profesionalidad de la dirección técnica para el desarrollo y materialización

algo que a través de los medios de comunicación hasta el propio lehendakari ha solicitado y de otro lado pedimos que la consejera de educación política lingüística y cultura comparezca en comisión a iniciativa propia

para que todos los representantes de la ciudadanía vasca en esta cámara

y también poder conocer las acciones y decisiones que se adoptan en la fundación donostia dos mil dieciséis con esta iniciativa lo que pretendemos

podamos tener información de las propuestas del gobierno vasco cómo se van a utilizar las redes los contactos del ámbito cultural vasco en beneficio de este proyecto estratégico queremos conocer en qué acciones concretas va a centrar su trabajo el gobierno vasco y queremos que se nos expliquen también

el porqué y la justificación de las decisiones que se adoptan en el seno de la fundación porque los parlamentarios y parlamentarias vascas

ajenos a este proyecto estamos en lo que se viene a llamar el tiempo de descuento por tanto las decisiones importantes se van a tener que poner en pista de un momento a otro

al menos así lo entendemos los socialistas que este parlamento conozca de primera mano

cómo se va desarrollando el proyecto este

ha servido en todo caso para desencadenar una serie de gestos y acciones por parte institucional que han buscado y encontrado

la declaración institucional del ayuntamiento de san sebastián dice que el pleno del ayuntamiento insta a todas las instituciones públicas que conforman la fundación a continuar trabajando desde el consenso y el acuerdo para dotar de los recursos necesarios para del desarrollo pleno del proyecto cultural en todas sus vertientes

del proyecto ganador cultura para la convivencia olas de energía ciudadana

en san sebastián y aprobado por el pleno por unanimidad hace ocho días

en esta cámara que representa a toda la ciudadanía vasca está demostrado que este proyecto tendrá éxito

complicidades si se hace partícipe a los demás grupos políticos informando y explicando de las decisiones que se adoptan

que hoy presentamos estamos convencidos que se abriría

muy sano e interesante en política porque se da transparencia al proyecto y será mucho más fácil buscar la implicación y el consenso de todos y todas en lo que respecta a la enmienda que había presentado el grupo nacionalistas vascos nosotros hemos considerado que los tres primeros puntos de esa enmienda ya estaban superados por la propuesta que aprobamos en el mes de febrero el veintisiete de febrero en esta cámara

que hemos considerado que el momento que estamos viviendo es un momento suficientemente

como para que se cambie y se modifique por lo tanto no entendíamos muy bien a qué venía esa enmienda pero bueno hemos intentado llegar a un acuerdo y a un consenso que no ha sido posible en los minutos previos a este pleno el ayuntamiento de san sebastián ha optado por un liderazgo compartido con el resto de grupos municipales para llevar a cabo adelante este proyecto

apoyamos esta decisión de lo que se trataba hoy aquí en este pleno

dar al gobierno o al menos instar al gobierno a tener unas determinadas pautas de actuación instándole a que se garantizara la profesionalidad de la dirección técnica del proyecto

en esta cámara de transparencia nos permitiese a los grupos políticos el seguimiento del día a día del trabajo que el gobierno vasco está realizando o pretende realizar para con el proyecto de la capitalidad europea dos mil dieciséis

no va a ser posible no va a ser posible que hoy la consejera se comprometa a comparecer

en la fundación y cuáles son las propuestas del gobierno vasco los socialistas hemos demostrado desde hace años que nos apasiona

de capitalidad europea de la cultura donostia dos mil dieciséis creímos en él desde el minuto uno como una oportunidad histórica para una ciudad para un territorio y para un país

y el jurado europeo convencido de nuestros propósitos nos dio esta magnífica oportunidad que no debiéramos dejar escapar y que tendríamos que aprovechar ya lo hemos dicho en varias ocasiones va a hacer falta

mucho trabajo y mucho tesón para conseguir culminar con éxito el proyecto de capitalidad europea san sebastián dos mil dieciséis un proyecto por el que los socialistas

porque de verdad creemos que la cultura y la educación son importantes elementos en ese mundo de los valores como instrumento de cambio

a ese gran reto actual de una europa de la europa de los estados de la europa de las ciudades de la europa de las regiones

de todos y todas qué tratamos de hacer aprender a vivir juntos gentes diferentes eso es el proyecto

dos mil dieciséis y espero de verdad que seamos capaces

de transparencia de búsqueda que nos permita buscar complicidades y que el gobierno crea que este parlamento tiene algo que decir algo que hacer

la complicidad de este parlamento no sería muy justo que los grupos políticos nos enterásemos de las cosas a través de los medios de comunicación y que después de verlo en los medios de comunicación tuviesemos que solicitar la comparecencia de la consejera para que nos contara en detalle

creo que el juego de la política permite otras no sé cómo decirlo otras jugadas mucho más interesantes más transparentes

porque de hecho el gobierno ya lo hace cuando el gobierno vasco tiene un plan de actuaciones o tiene determinadas iniciativas que plantear en otras instituciones incluso viene a este parlamento el consejero o la consejera de turno viene

y explica cuáles son sus planes cuáles son sus trabajos o los trabajos que pretende hacer y a mí me gustaría saber por qué en este caso eso no es posible

sí muchas gracias presidenta yo a veces tengo el problema

en más bien pocos segundos si firmar determinadas transaccionales que se me trasladan

no ha sido este exactamente el caso pero sí que a veces tengo ciertamente la duda de si firmar algunas transaccionales que otros grupos me proponen y es habitual

a los que han firmado esa transaccional o a los que están dispuestos a firmar esa transaccional

ciencia cierta si merece la pena mojarme con la firma de una transaccional específica y en este caso concreto lo cierto es que el señor sémper me ha ofrecido una transaccional y yo tenía dudas de si firmarla o no

contundente o quizás que se podía quedar corta para lo que en estos momentos exige la ciudadanía en general y la sociedad donostiarra

y al señor sémper yo estaría dispuesto a firmar esta transaccional porque creo que es importante que especialmente ustedes mantengan un tono crítico en relación a esta cuestión y no se queden exclusivamente

hace escasos días en el ayuntamiento de san sebastián por lo tanto puesto que he observado que en ustedes se mantiene la crítica hacia lo que se está haciendo

yo estaría dispuesto a firmar esta transaccional y en todo caso a votarla nosotros en todo caso vistas las mociones presentadas habíamos presentado una enmienda que pretendía ser digamos más exigente más contundente quizás

se nos señalaba desde la representante de eh bildu sino una enmienda que intente también porque creo que es importante en este asunto llamar a las cosas por su nombre y tratar de calificar qué es lo que está ocurriendo con este proyecto y qué es lo que podría hacerse

exigiera a todas las instituciones competentes y que se comprometiera también él mismo a impulsar todas las acciones necesarias para hacer posible que el proyecto san sebastián dos mil dieciséis tenga éxito y logre alcanzar los objetivos fundacionales básicamente reforzar los lazos culturales europeos para lo que es imprescindible rescatar el proyecto que es una expresión que utilizo acertadamente el portavoz del gobierno vasco acabar con el sectarismo una expresión que algún grupo me ha pedido que la retirase yo prefiero llamar a las cosas por su nombre porque es lo que impera

de este proyecto asegurar un liderazgo hoy día inexistente porque creo que compartimos todos que no hay liderazgo y evidentemente favorecer la participación ciudadana garantizar la transparencia involucrar e ilusionar y comunicar

solvente independiente y experimentado lograr una financiación suficiente y configurar un programa cultural de nivel ambicioso y cosmopolita y

lo que planteaba con acierto el grupo socialista a través su moción como dice por lo tanto el punto uno de nuestra enmienda el objetivo sería alcanzar los objetivos fundacionales u originarios esto es que este proyecto logre destacar la riqueza y la diversidad de las culturas europeas y las características que comparten

un mayor conocimiento y entendimiento mutuos entre los ciudadanos de europa este sería el objetivo originario y el fundamental y obviamente que este proyecto sirva al conjunto de los ciudadanos les aporte les sea útil y sirva también para beneficio de san sebastián de gipuzkoa y de euskadi estamos de acuerdo con una declaraciones recientes realizadas por el portavoz del gobierno se trata de rescatar el proyecto

que inicialmente ilusionó a buena parte de la ciudadanía camina hacia el fracaso más absoluto y esto debe decirse si no se hace nada si esto no se cambia el fracaso

consecuencia y hay que decirlo principalmente del sectarismo y de la ineptitud y de la incapacidad de bildu y de la complicidad también del partido nacionalista vasco pero también de que algunos otros partidos políticos y determinadas instituciones no han hecho todo lo posible para tratar de corregir o impedir determinadas decisiones tomadas

exigir que se cumplan las recomendaciones realizadas en su momento por el comité de seguimiento y asesoría para la capital europea de la cultura emitido en octubre de dos mil trece

estado hoy día el proyecto se ha convertido en una carrera de despropósitos que evidencia la incapacidad y el sectarismo de bildu pero que nos dejará internacionalmente en ridículo a todos especialmente si no denunciamos lo que está pasando se multiplica las dimisiones se pospone las decisiones una absoluta y patética falta de liderazgo se evidencia una falta palmaria de iniciativa y de ideas e incluso una falta de voluntad de que este proyecto llegue a buen puerto evidentemente el máximo responsable es bildu pero si bildu no sabe no puede o no quiere

sí podemos y sí queremos y obrar en consecuencia y esto evidentemente no es interferencia política esto creo yo que es actuar con responsabilidad como decía el principal responsable es bildu pero no podemos olvidar la complicidad del partido nacionalista vasco en los últimos meses hay que

para su financiación hay que actuar de manera seria responsable y profesional hay que ilusionar a la ciudadanía hay que actuar con transparencia hay que recuperar se ha dicho el espíritu original del proyecto y elegir a los mejores para que tiren de este proyecto para que pueda ser efectivamente de todos y tengan

se trata de proyectar lo mejor de euskadi no lo peor de euskadi o a los peores de euskadi si el partido nacionalista vasco hubiera impedido que bildu gobernara en el ayuntamiento de san sebastián o que gobernara en la diputación foral de gipuzkoa es evidente que hoy no estaríamos como estamos es bastante

está la responsabilidad del partido nacionalista vasco que prefiere dejar hacer a bildu a la espera de que los resultados electorales del próximo año le acompañe esta es la responsabilidad por lo tanto directísima del partido

en este caso no se han movido más que en una dirección que ellos consideran les puede interesar de manera partidaria lo cierto es que hay un gran retraso

no hay proyecto cultural no hay nada para implicar a la ciudadanía no hay liderazgo no hay política de comunicación no hay estabilidad

decía la consejera que el gobierno vasco hará cuanto este en su mano para sacar adelante este proyecto cultural y social lo cierto es que hasta ahora no lo ha hecho y ciertamente lo explicaba bien la señora corcuera en su interpelación cuando la consejera le decía a la representante del grupo socialista hoy prevalecen la desafección ciudadana y el distanciamiento de la sociedad y todo lo demás que la mayoría de nosotros hemos descrito abogar por más consenso o quedarnos en simples declaraciones

es un error como es un error enterrar la crítica política en aras del consenso y me refiero incluso a la crítica propia de algunos partidos políticos generosidad sí pero crítica y exigencia también creo que

era mejorable quizás se queda corta pero ya digo que

y puesto que mantienen una critica a lo que se está haciendo nosotros estaríamos dispuestos a firmar esta

que los grupos municipales vascos o del ayuntamiento de san sebastián firmen una declaración institucional conjunta y comparezcan ante los medios todos juntos no aporta nada porque no hay nada detrás salvo quiero pensar crítica y disenso y en este caso es bueno que haya crítica y que haya también disenso

de que las cosas pueden cambiar de hecho hoy la representante de eh bildu ha reivindicado esa declaración institucional del ayuntamiento de san sebastián esa foto conjunta para decir que este asunto no debe tratarse en este parlamento por eso hay que tener mucho cuidado qué declaraciones institucionales se firman con quién y qué fotos

en todo caso ya digo que nosotros estaríamos dispuestos

esa transaccional decía eh bildu que no tienen sentido estas mociones y no quiere que hablemosen este parlamento de una cuestión que nos afecta a todos e incluso dice que no le parece apropiado pedir a la consejera de educación que comparezca en esta cámara para dar explicaciones esto yo creo que evidencia muy claramente

pretende que todos los demás grupos nos mantengamos callados en fin vista la transaccional por lo tanto y las intervenciones estaríamos dispuestos a firmarla y

porque pide algunas cosas interesantes en los puntos uno dos y tres y porque exige y esto nos parece muy interesante exige a la consejera que pueda comparecer en esta
cámara con el fin de dar cuenta de aquello que se trata en las reuniones concernientes a este asunto maneiro jauna amaitzen joan mesedez sí muchas gracias presidenta ya termino

le recuerdo que las decisiones son competencia de las instituciones competentes y no solo del gobierno vasco en dichas instituciones con absoluta transparencia y notoriedad

no se va a comprometer hoy a comparecer ahora sobre este tema porque ya se ha comprometido en una ocasión anterior la consejera ya está comprometida

usted ha dicho que nuestra enmienda está ya pasada

es una adecuación de los tres puntos de la declaración institucional del ayuntamiento de donosti y más actualidad que eso no creo que haya

señor maneiro así como en ocasiones soy muy critico con usted bueno se supone que el parlamentarismo debe de también ser eso en esta ocasión tengo que

venimos aquí para escucharnos y lo razonable lo esperable lo ideal sería que en función de lo que oímos pues podamos modular nuestras posiciones o incluso alterar el sentido de un voto eso sería

parte de la esencia del parlamentarismo que las réplicas duraran más que las intervenciones iniciales porque hay que responder a tanta gente que al final

al resto y tienes la oportunidad de discutir confiemos en que el reglamento sea modificado en breve y eso suceda a mí juicio

el origen del problema que tenemos ahora o de la situación en la que nos encontramos y es que debemos de pasar

de la retórica a la exigencia debemos de pasar de palabras biensonantes de

a la exigencia porque la situación lo requiere

pues son compromiso unánime y entusiasta de todos los grupos políticos por sacar adelante el proyecto de san sebastián dos mil dieciséis desde el consenso político y la participación ciudadana por encima de cualquier sigla o lectura política

participación de todos los grupos políticos para superar las dificultades actuales

de estabilidad del equipo técnico para conseguir que el proyecto cultural se desarrolle con éxito desde el acuerdo de la excelencia cultural y la participación y el orgullo ahí es nada y el orgullo ciudadano y bla bla bla esto está mal no si esto es estupendo

lo obvio no es malo lo que creemos que ya basta de retórica y de acuerdo sobre lo obvio porque los acontecimientos los hechos nos demuestran que mucho acordar sobre lo obvio

ahora tenemos que pasar sin sin ninguna dilación a la exigencia contundente

permanente de la gestión del proyecto de capitalidad san sebastián donostia dos mil dieciséis poniendo especial énfasis en la gestión del patronato

presidido por el alcalde de san sebastián y por eso es fundamental el papel del gobierno vasco porque está presente en ese patronato

del trabajo de ese patronato por eso tenemos que poner hoy a nuestro juicio el acento

no en lo bien sonante no en la retórica en la que es fácil coincidir que está bien pero que ya no sirve porque

señora breñas usted hablaba por encima de todo partidismo al margen de hechos políticos el alcalde ha dicho que va a trabajar por recuperar la ilusión de hace tres años no se puede poner en cuestión la profesionalidad del equipo técnico aunque sea bueno cómo no vamos a poder en cuestión la profesionalidad en todo caso el acierto del equipo técnico si los resultados

cómo no vamos a ponerlo en cuestión dejémonos ya de eufemismos qué es esa apelación a por encima de todo partidismo pero quién ha hecho partidismo de este proyecto

por encima de todo partidismo por encima de intencionalidades políticas partidarias pero quién ha hecho partidismo de esto a mí me gustaría que alguien fuera capaz de decir mire el partido socialista el partido nacionalista vasco el partido popular han hecho partidismo con el proyecto de capitalidad cultural de esta manera y de esta otra si no ha habido si no ha existido

porque es verdad señora breñas y le reconozco y pido disculpas a esta cámara por haberlo dicho antes de la manera en la que lo he dicho porque he dejado no he identificado y no me gusta hablar sobre rumores

el alcalde de san sebastián le dijo al portavoz del grupo municipal en san sebastián a ramón gómez que la izquierda abertzale nada más llegar al ayuntamiento que la izquierda abertzale no creía en este proyecto

en la dirección técnica del proyecto más expreso

y los acontecimientos posteriores confirman esto porque los nombramientos que tanto la diputación foral de gipuzkoa como el ayuntamiento de san sebastián fueron haciendo para la dirección técnica del proyecto

eso es una realidad objetiva y cuando se busca perfil político en lugar de un perfil técnico probablemente habrá casos en los que coincida la excelencia pero no suele ser lo habitual

buscar a los mejores independientemente de a quién votaran o cómo se apellidaran y eso no ha sucedido y claro un mínimo de autocrítica

estaría bien también por parte de bildu porque alguna responsabilidad tienen ustedes

del proyecto de la capitalidad san sebastián dos mil dieciséis y brilla por su ausencia pero no quiero regodearme en eso pero es que

los errores del pasado a futuro al menos hablemos con claridad de cuáles han sido los errores

para intentar acomodar el proyecto a sus intereses a través

de la introducción de determinadas personas en la dirección del proyecto

que usted no lo comparte y cree que eso se tiene que acabar pues acabemos con ellos

creo que en breve va a ver una reunión del patronato y deberían de ponerse

de excelencia a la hora de buscar a la dirección del proyecto cultural de la dirección general eskerrik asko sémper jauna debería buscarse a los mejores en cualquier lugar del mundo para que este proyecto sea un éxito que es lo que

gracias presidenta vamos a ver el pasado once de abril tras la interpelación

ella misma nos decía que el trabajo se iba a desarrollaren torno

el consenso institucional político y social la comunicación

tener en la fundación o también en el ámbito

vasca porque sería más que conveniente de todo punto de vista que la consejera tuviese la iniciativa de comparecer de motu propio

de la fundación donostia dos mil dieciséis porque comparecer en comisión en este parlamento

hace el gobierno vasco cuando tiene iniciativas acciones o trabajos que quiere dar a conocer y busca el compartir el encontrar complicidades

porque estamos hablando de un proyecto estratégico para toda euskadi no estamos hablando de un proyecto exclusivamente para san sebastián estamos hablando de un proyecto para toda euskadi

en ese proyecto que tiene que tener el ayuntamiento de donostia san sebastián pero cuando el gobierno vasco está en esa fundación es porque también hay un ámbito vasco en el cual ese proyecto por la convivencia tiene que desarrollarse y lo que no es de recibo es que en esta cámara tras lo ocurrido durante el mes de abril en el que ha habido

ceses dimisiones del equipo técnico del corazón de ese proyecto que lo tiene que llevar adelante no es de recibo que la consejera pretenda que le solicitemos la comparecencia para que nos explique cuáles son los trabajos que pretende llevar a esa fundación

le decía es que cuando este parlamento abra el periódico

según lo que plantea usted en su enmienda transaccional es que cómo si no nos vamos a enterar de que la fundación se ha reunido en este parlamento

en qué fecha se ha reunido la fundación donostia dos mil dieciséis es que cree usted de verdad

tan grave es que una consejera acuda de motu propio a este parlamento

de qué intenciones tiene el gobierno vasco para el proyecto de la capitalidad europea para buscar complicidades

para buscar implicaciones también de este parlamento que también las tiene que también las tiene este parlamento no es ajeno al proyecto de la capitalidad

que las instituciones deben ejercer con respecto a este proyecto porque este parlamento y las juntas generales de gipuzkoa tienen el deber de controlar e impulsar la labor del gobierno y en este caso ante un proyecto estratégico los grupos parlamentarios tenemos mucho que decir los grupos parlamentarios del ámbito vasco faltaría más

el que no quiera proponer el que no quiera oír a la consejera pues que no venga a la cámara que no venga a esa comisión pero que deje a los demás partidos políticos

cuando de motu propio y en un ejercicio de transparencia y de pedagogía que ya hace falta que ya hace falta también en este tema es necesario que la consejera venga es que yo no sé dónde está el miedo dónde está el problema dónde está el hecho de que no venga

es que ya lo hemos aprobado y creo que la señora breñas también y si no discúlpeme decía es que ya lo aprobamos el veintisiete de febrero

es que la consejera compareciera como mínimo una vez en cada periodo de sesiones pero es que era el veintisiete de febrero veintisiete de febrero y es que un mes después

que desaparece el equipo técnico de la fundación el equipo que va a desarrollar el proyecto estratégico de la capitalidad europea esa es la diferencia entre febrero a ver si nos va quedando claro y cuando resulta que se dinamita

el corazón técnico de ese proyecto yo creo que es más que razonable que se esté pidiendo por parte de los grupos políticos un gesto y en este caso al gobierno vasco porque el ayuntamiento de san sebastián ya ha hecho autocrítica el alcalde

cuando le pedía y le decía que no había habido liderazgo ha sido esta parlamentaria pero sí le reconozco la autocrítica y el gesto que ha tenido

con respecto al proyecto de capitalidad tiene otro proyecto y por lo tanto tiene perdón otras funcionalidades en ese proyecto y lo que le estoy solicitando es que venga y nos lo cuente

intentaremos buscar en el periódico el día que se haya reunido la fundación

yo creo que es mucho más importante si usted está buscando las complicidades si usted está buscando el consenso y me consta que lo quiere tenga el gesto

sí gracias presidenta no manipular no manipulo nada escucho lo que usted ha dicho

y proponen y firman una transaccional que lo que viene es a decir que ya se firmó una declaración institucional el pasado martes que básicamente no decía nada y por lo tanto no es conveniente que sigamos hablando de esta cuestión en este parlamento y a la hora de votar y de firmar una transaccional tampoco consideran conveniente que la consejera

pueda comparecer en comisión tantas veces como sea necesario para explicar qué es en lo que esas reuniones dicen o se basan ahí están los hechos ahí está la transaccional que ustedes han firmado evidentemente tenemos un grave problema que es el futuro de san sebastián dos mil dieciséis no sabemos qué es lo que va a ocurrir pero sabemos a ciencia cierta lo que se ha hecho hasta ahora

que iba bien y lo que se ha desarrollado después y lo que tenemos a día de hoy que es una cadena de despropósitos que demuestran evidentemente la incapacidad la ineptitud el sectarismo

y de todos los que le rodean se demuestra la incapacidad la ineptitud no tienen ustedes capacidad de desarrollar nada que sea serio y beneficioso para los ciudadanos no es que ya no crean en este proyecto sino que

con él salvo llevarlo a la deriva y ciertamente por alguna decisión que ustedes han tomado más bien podríamos pensar eso que lo que ustedes pretenden es que este proyecto no tenga éxito y fracase absolutamente

en el ayuntamiento de san sebastián el pasado martes la utilizan la han utilizado tanto bildu como el partido nacionalista vasco para tratar de sacar provecho y decirles algo así como que no hagan nada más que ya firmamos aquella declaración

determinadas fotos determinados supuestos consensos no vienen bien para nada sino más bien para todo lo contrario y nosotros en este caso desde luego evidentemente pensamos que basta ya de retórica como decía el

hay que pasar a la exigencia hay que pasar al control hay que pasar al compromiso hay que pasar a la crítica y hay que pasar al disenso sí al disenso

aunque nos acusen de querer confrontar que nos acusen

no es cuestión de querer confrontar sino de plantear una alternativa a todo lo que se ha venido haciendo por lo tanto es evidente que a día de hoy nos movemos en la posibilidad de que este proyecto se convierta en un fracaso absoluto a pesar de que

siguen trabajando siguen trabajando para no hacer nada y para seguir tomando decisiones absolutamente equivocadas y es un hecho evidente que el partido nacionalista vasco sigue sin querer enfrentarse a la izquierda abertzale

que es un activo bastante importante del partido nacionalista vasco en gipuzkoa y la pretensión evidente en todas las decisiones que se toman en el ayuntamiento de san sebastián o en gipuzkoa la pretensión de no incomodar a la izquierda abertzale por parte del partido nacionalista vasco

en el bloque españolista esperando buenos resultados en las próximas elecciones pero eso es un hecho cierto ahí el máximo responsable sería

que en lugar de observar qué es lo que necesitan los ciudadanos está pensando

para recuperar el poder en el ayuntamiento de san sebastián o alcanzarlo y recuperar el poder en la diputación foral de gipuzkoa en el fondo yo creo que es esto también lo que marca el debate en relación al proyecto

dos mil dieciséis que el partido nacionalista vasco prefiere mirar para otro lado y en este caso concreto pretende firmar la transaccional que han firmado con

finalmente votaremos a favor de la transaccional que han firmado

y de pliegos pero en su propuesta no aparece ni lo uno ni lo otro

únicamente de profesionalidad en la dirección técnica por tanto no vemos nada nuevo sobre lo ya acordado tanto en este parlamento como en el ayuntamiento donostiarra ni en la cuestión referida a la profesionalidad de la dirección técnica

incluida la búsqueda de complicidades para impulsar el proyecto señor maneiro todo lo que usted ha dicho nos parece un exceso con el único objetivo de buscar titulares no estoy

no estoy ni de acuerdo con eso porque el señor egibar es un activo muy importante

de donostia dos mil dieciséis parece isiltasuna mesedez el problema más grave de donostia dos mil dieciséis

es el problema más grave que tiene el proyecto dos mil dieciséis según le hemos escuchado a usted porque en su turno de réplica ha dejado claro que su único interés hoy era un interés personal y partidista

como parlamentaria para obtener información del gobierno sea que la consejera pida comparecer de motu propio

porque el que la consejera venga a dar explicaciones de los acuerdos adoptados o de las propuestas planteadas en las reuniones de la fundación no tiene ninguna incidencia

no aporta nada al objetivo de conseguir que el proyecto sea un proyecto exitoso adecuado especial lo que quiera además no aporta absolutamente ningún plus

porque allí decía y le leo hitzez hitz el parlamento vasco insta a la consejera de educación cultura y política lingüística a comparecer

al objeto de informar sobre el desarrollo y avance de la iniciativa y no aporta nada mucho menos aún después del acuerdo

dejemos que este acuerdo se desarrolle de una forma natural sin más injerencias que lo único que pueden hacer sea dificultar el proceso acordado por todos y le repito que la consejera

y no según sus intereses personales o partidistas eskerrik asko eskerrik asko mendizabal andrea mesedez isiltasuna

sí muchas gracias presidenta interpelado el señor lehendakari sobre la cuestión y vista la respuesta y visto que el gobierno no pretende dar un rumbo diferente a lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos en relación a lo que se llama como paz y convivencia

y puesto que se mantiene en sus trece de no variar el rumbo a pesar de que hay varios partidos políticos

que creo que también por otro lado es bastante clara bastante contundente pero también bastante concreta y concisa porque resume perfectamente qué es lo que queremos nosotros proponemos instar al gobierno vasco a conformar un nuevo equipo compuesto por personas reconocidas por su trayectoria de apoyo a las víctimas del terrorismo

y que tenga como objetivos fundamentales garantizar la reparación la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo contar el relato cierto de los hechos ocurridos

impedir la impunidad de los criminales y elaborar y consensuar evidentemente con los partidos políticos democráticos un nuevo plan que deslegitime la historia

y que desarrolle acciones transversales que sustenten y defiendan los principios democráticos y la convivencia democrática en el seno de la sociedad vasca

es decir pedimos la disolución de la actual secretaría general de paz y convivencia y la elección de un nuevo equipo con nuevos nombres que den un rumbo diferente a la política del gobierno en esta cuestión evidentemente aquí también está directamente afectado el señor lehendakari como máximo responsable

olvidarlo por lo tanto nuevos nombres que sustituyan a los nombres actuales efectivamente tal como se nos dijo desde el grupo

que únicamente apoyó upyd a través de una enmienda no se trata solo de nombres pero en nuestra opinión los nombres son fundamentales

se ha visto por lo tanto nuevos nombres y evidentemente como en otros asuntos proponemos y pedimos que esas personas a elegir sean personas

de reconocida trayectoria personas que hayan destacado por su apoyo a las víctimas del terrorismo nuevos nombres y nuevo rumbo

del gobierno vasco tal como propone también el grupo socialista en su enmienda

reconducir su política nosotros lo concretamos señalando los objetivos señalados en esa moción garantizar la reparación la memoria y la dignidad

del terrorismo contar el relato cierto de los hechos ocurridos atenderlas como merecen hacer justicia impedir la impunidad de los criminales y elaborar un nuevo plan de paz y convivencia cuyo cambio por cierto inicial debería ser el propio

presentada la moción nosotros estábamos ciertamente deseosos de observar atentamente las aportaciones del resto de partidos políticos para comprobar

está de acuerdo con nuestra propuesta pero añade acertadamente un nuevo punto consistente en instar a que realice a través de una comparecencia ante el pleno del parlamento un informe en el que se concreten los cambios exigidos

en lo que se refiere a los nombres y en lo que se refiere a los objetivos de la secretaría general

porque no hace demasiados meses ya digo que el partido popular no apoyó una enmienda nuestra en la que proponíamos pedir directamente la dimisión del señor jonan fernández precisamente para poder dar un nuevo rumbo a esa secretaría general y convivencia ahora el partido popular se une a upyd para pedir de un nuevo equipo que seguramente no es suficiente pero en todo caso es necesario y en relación a la enmienda del grupo socialista debo confesar que sentíamos una gran curiosidad para comprobar qué es lo que el grupo socialista iba a presentar

en el momento en que se produjo por ejemplo sin ir más lejos el cese o la destitución del señor urkijo

atentos a ver qué era lo que se proponía a través de esa enmienda y vista la enmienda socialista creo que

y su enmienda es la necesidad de conformar un nuevo equipo y elegir a unas nuevas personas no digo que no sea una diferencia importante de hecho

de transacción pero por lo demás podíamos estar básicamente de acuerdo lo que ocurre es que para nosotros es irrenunciable pedir la conformación de un nuevo equipo y de nuevas personas que tracen un nuevo rumbo en la política del gobierno en relación

el grupo socialista por qué no consideran necesario elegir un nuevo equipo efectivamente es el gobierno

gobierno tomará en consideración nuestra petición pues ya estaríamos asistiendo a un cambio de rumbo en todo caso nuestra obligación creemos que era exigírselo nosotros ofrecimos al grupo socialista una enmienda de transacción y al grupo popular finalmente ha sido rechazada por el grupo socialista porque incluíamos ahí la elección de un nuevo equipo por lo demás prácticamente copiábamos de manera literal la enmienda de totalidad del grupo socialista incluido aquello de reforzar el suelo

por cierto eso también lo incluíamos finalmente hemos firmado una transaccional con el grupo popular que es un sumatorio de la iniciativa original

enmienda tenemos claro que el gobierno y el lehendakari y la secretaría general de paz y convivencia van por muy mal camino

gravemente evidentemente se están equivocando voluntariamente están tomando decisiones claramente equivocadas y no están situando a las víctimas del terrorismo

no están contentas ni mucho menos con las actuaciones llevadas a cabo por este gobierno la propia elección del señor jonan fernández para dirigir la secretaría general de paz y convivencia

la inacción del gobierno en lo que se refiere a medidas concretas para aclarar los crímenes cometidos por eta pendientes de resolución la pretensión del gobierno de incluir

el terrorismo de eta las obsesiones del gobierno en lo que se refiere a la política penitenciaria del gobierno de españa el papelón

y de la no entrega de armas legitimando una actuación insultante para las víctimas del terrorismo las propias declaraciones del señor jonan fernández aquellos días cuando acusó al gobierno de españa de someter a la sociedad vasca a un estado de convulsión

en fin son estos hechos y otros muchos hechos ocurridos durante todos estos meses lo que nos ha obligado a presentar aquella interpelación y esta moción ojalá se hubiera sumado el grupo socialista a esta enmienda de transacción en todo caso nosotros lo que pedimos es la disolución

la elección de un nuevo equipo con personas solventes

evidente de apoyo a las víctimas del terrorismo y un nuevo rumbo en la política del gobierno vasco y en concreto del propio lehendakari nada más y gracias

señor lehendakari señora consejera buenos días nosotros también creemos que es necesario un cambio urgente una rectificación

en el rumbo de la secretaria general de paz y convivencia después de casi año y medio de andadura son más las sombras que las luces en su trayectoria

la inquietud manifestada por el señor maneiro en su moción ya lo manifestamos nosotros también hace unas semanas en el pleno de control que tuvimos en el parlamento con una pregunta que realizábamosal señor lehendakari una frase creo que falta un gesto relevante y notorio de este gobierno del gobierno vasco

contundente y demostrativa de una determinada actitud calificó el cesado asesor de la secretaría general de paz y convivencia del gobierno vasco el señor urkijo la posición

social esta frase es innegable ha producido una crisis importante y una

en la secretaría general de paz y convivencia y eso esa crisis y ese desprestigio afecta

eso es innegable para que esta reflexión se haga por el asesor de víctimas es que algo

en la secretaría general de paz y convivencia el papel de esta secretaría general no ha sido coherente con su título

con muchas aportaciones recibidas al documento inicial del plan de paz y convivencia y que recordaban muchos olvidos en ese plan

para criticar las políticas del gobierno de españa apoyo a los planteamientos y actuaciones de extraños intermediadores

deficiente gestión con problemas añadido a las asociaciones de las subvenciones a quienes trabajan por los derechos humanos retrasos e impagos

actitudes colaboradoras con asociaciones como etxerat y ahora la falta de gestos con las víctimas del terrorismo según

de un exmiembro de la propia secretaría general señor lehendakari señorías saltan por los aires los compromisos y los objetivos

saltan por los aires los compromisos los objetivos de esa ficha cuatro en relación con las víctimas del terrorismo saltan por los aires los compromisos

llamados denominados microacuerdos uno y dos en relación con el compromiso ético y con el compromiso político aquí ha habido mucha estética pero ha habido y hay una clamorosa patética lamentable falta de autenticidad recordamos la ficha cuatro en relación con los objetivos apoyo

individualizada a las víctimas a fin de conocer en cada caso sus necesidades e informales de los derechos reconocimiento apoyo impulsar aquellas iniciativas y actividades tendentes a hacer efectivo los derechos de las víctimas de terrorismo de todas las vulneraciones de lo hecho

estas cuestiones con la frase con el planteamiento del señor urkijo saltaron por los aires

una cuestión cantada en relación con la trayectoria con las actuaciones de la secretaría general hasta ese momento y la estrategia en la que se movía y desde luego los

en ese alarde de originalidad del señor fernández microacuerdos para esta legislatura esos han saltado por los aires en relación con una propuesta de compromiso ético

falta si el gobierno vasco falta si el lehendakari no tiene ese gesto que se exigía desde precisamente el interior

del compromiso de las víctimas en la secretaría general el que debía de serlo de paz y convivencia y desde luego salta por los aires una propuesta de compromiso político por un marco de confianza en el presente donde se decía que nos comprometemos a que la memoria y el honor de las víctimas no queden relegadas por una mirada al futuro que se olvida del pasado pues vuelve a faltar y vuelve a saltar por los aires

pasado y el de presente en esa cuestión queda ciertamente neutralizado por esa actuación está claro que en ese sentido

otra forma otra posibilidad más que entender que es el cambio de rumbo la ciaboga es lo que debe de producirse en esa secretaría general y

esa enmienda de transacción en relación con instar al gobierno vasco

enmienda de transacción conformar un nuevo equipo compuesto por personas reconocidas por su trayectoria al apoyo de las víctimas del terrorismo que sustituya al actual equipo

garantizar la reparación la memoria la dignidad de las víctimas del terrorismo contar el relato cierto de los hechos ocurridos atender a las víctimas como requieren y merecen hacer justicia

que deslegitime la historia y las ideas totalitarias defendidas por eta y que desarrolle acciones transversales que sustenten y definan los principios democráticos y la convivencia democrática en el seño de la sociedad vasca efectivamente en esta cuestión hemos añadido un punto en nuestra enmienda

consideramos que es una cuestión fundamental y entendemos ya lo dijimos desde luego en el debate de aquella

un relevo en la actual secretaría general de paz y convivencia muchas gracias eskerrik asko barrio jauna eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza

ekartzea herri honetara baizik eta gatazkaren parametroetan berriro ere kokatzea se suele decir que quien solo tiene martillos en su caja de herramientas todos los problemas le parecen clavos hoy los dos proponentes en la transaccional

no nos traen un diseño de convivencia ni nos traen un programa que acerque la normalización política nos traen una iniciativa

a clave antiterrorista relato cierto impunidad partidos democráticos frente a ideas totalitarias es decir lo

una propuesta que podía estar incardinada en aquellos momentos duros en aquellos denominados años de plomo en épocas que si no dejamos atrás más rápidamente es precisamente por los obstáculos que proponente o más en concreto

en poner ustedes nuevamente nos traen una propuesta soportada en esa lógica de los vencedores y vencidos sobre la visión de una

de un único colectivo de víctimas como resultado de ella sobre la lectura de un único relato que para ser veraz además el suyo y que además mira para otro lado ante los crímenes del estado crímenes que también

a sus responsables nos traen un plan en clave antiterrorista de pretéritas épocas antiterroristas lo único que tienen a mano como decía solo tienen martillos en su caja de herramientas no da para más ez dugu espekulatuko

nahi dugu consideramos falso ese debate de los equilibrios supuestas proximidades o distancias subjetivas entre víctimas de hecho

sin falsas equidistancias una expresión confusa

de manera imperativa complicidades hacia las víctimas de una violencia concreta mientras que instaba por decreto al alejamiento la marginación

víctimas lejos de ese planteamiento subjetivo escorado proponemos establecer parámetros objetivos de tratamiento igualitario a todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos estas deben de ser tratadas con recursos equivalentes con similares medios tal y como iguales son a la verdad y a la justicia con iguales a acceso al reconocimiento y reparación y estableciendo los mecanismos necesarios

establece que la víctima de una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos tendrá un acceso igual

igual a un recurso judicial efectivo indica además otros recursos de que dispone la víctima en el acceso a órganos

modalidades y procedimientos es decir a lo que hoy en día nos estamos refiriendo dentro de las iniciativas y de las acciones del plan de

igualdad de acceso como digo el principio quince prescribe que la reparación adecuada efectiva y rápida

promover la justicia la reparación a de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y el daño sufrido recursos en definitiva que se deben poner en manos de víctimas por igual consideramos que tiene que terminar ese dualismo de trato

estándar un trato desigual que demanda políticas relatos gestos hacia unas víctimas mientras se niegan otras un acceso discriminatorio a la justicia a ayudas a reparaciones que margina a víctimas incómodas un trato

diferentes varas de medir superar esa fase y buscar un tratamiento igual para toda víctima es lo que demandamos se materialice por parte del